arratsalde on gracias presidenta bien el grupo socialista propone en este día

y esta lo es las históricas las que nos han hecho llegar a donde estamos las que han permitido hacer la euskadi social y la euskadi plural y nos parece

en estos momentos en los que se están cuestionando los pilares esenciales sobre los que se ha ido construyendo esta sociedad una forma de convivir

y un modelo a actualizar a ponerlo al día estas son las tres cuestiones básicas que se incluyen en esta proposición

que en esos términos se han venido refrendando por una inmensa mayoría de esta cámara hasta el día de hoy no traemos una idea socialista de cómo debe ser nuestro autogobierno

que consiguió sumar desde el principio a comunistas y centristas y que en sus cuarenta años de recorrido ha ido sumando más voluntades porque todos

la comisión de expertos nos trasladará un texto articulado sobre las bases que pactaron básicamente dos fuerzas partido nacionalista vasco y euskal herria bildu

la responsabilidad política vendrá después si cada grupo acepta o no como base ese texto para registrar una proposición de ley y aquí sí quiero recordar la posición socialista que es para que no quede duda que no asumimos como punto de partida

ni ninguna interpretación que derive de establecer categorías ciudadanas en lo demás trabajaremos por profundizar en las muchas coincidencias que como hemos venido insistiendo repetidamente en la ponencia de autogobierno son muchas más que los aspectos que nos separan

debe ser la garantía de los derechos sociales que hemos conquistado la garantía de pluralidad la garantía de legalidad que es lo que hace que todo lo demás sea viable nos parecen los tres pilares esenciales lo que nos ha hecho llegar hasta este día y que el estatuto

lo que hoy queremos compartir y hemos visto las enmiendas presentadas por otros grupos a nuestra iniciativa vemos a un partido popular que se quiere quedar donde estamos

como se ha hecho en el resto de las comunidades salvo la nuestra porque quiero recordar que es el único estatuto de autonomía que desde su aprobación no ha tenido ningún proceso de reforma vemos a una euskal herria bildu que como insiste donde puede huye de dónde ha huido siempre por cierto

por no haber estado en todos los años en los que se fue construyendo esta euskadi

sobre este mismo asunto han pactado otras cosas aquí

y algunos han cambiado también de posición los socialistas décimos aquí lo mismo que en el ayuntamiento de bilbao o en el de vitoria lo mismo que en las juntas generales y lo hacemos con la firme voluntad en todas las instituciones

que ya habrá tiempo sino sobre los acuerdos ya trabajados con anterioridad de eso queremos hablar

ha sido y es el mejor pacto que los vascos hemos sabido hacer hasta ahora para progresar juntos el mejor pacto entre nosotros

hayamos hecho con el resto de españa es el mejor instrumento que hemos sabido encontrar para lograr la mayor transformación que nunca haya logrado euskadi y ese pacto

a cada intento de ser laminado y al intento permanente de eta de acabar con él porque no es baladí que fuera justo después de la aprobación del estatuto

su acción terrorista cuando eta ha matado más ha perseguido más ha amenazado más es cuando

o la escuela pública vasca o la normalización del euskera o el derecho a una renta de garantía de ingresos

y hemos conseguido que incluso quienes hace cuarenta años se opusieron al estatuto

o reclamen su desarrollo los socialistas también nos sumamos a esa reivindicación también creemos que tenemos capacidades por explorar y acuerdos por culminar y nos sumamos al criterio que el gobierno vasco explicó cuando a principios de este año el gobierno de españa

y pactado de ese autogobierno tal y como recogemos en nuestra proposición un compromiso en vigor que confiamos que tenga un cauce posible el de desbloquear por fin la gobernabilidad del conjunto del país lo mismo que reiteramos nuestro compromiso en modernizar ese autogobierno

y hacerlo tal como se ha acordado en este parlamento dentro de la legalidad pero este aniversario redondo merece además compromisos de futuro

por qué estamos aquí por qué somos parlamentarias y parlamentarios miembros del gobierno vasco por qué la ciudadanía se siente segura en un espacio en el que nacionalistas y no nacionalistas nos ponemos de acuerdo en desarrollar políticas al servicio

y pensamos que ese es el espíritu que de verdad impregna nuestro actual estatuto

la reivindicación del logro conquistado sobre lo que soñaron nuestros mayores una euskadi donde quepamos todos esta iniciativa por tanto no nace contra nadie nace desde el país construido juntos y desde los compromisos adquiridos

un país juntos y en esta euskadi todas las instituciones públicas tenemos que ser partícipes de este espacio compartido por eso planteamos esta declaración

es cierto que los socialistas nos sentimos orgullosos de formar parte de todo lo que aquí se recoge pero lo que hacemos es en cada párrafo ratificarnos en acuerdos

por eso pedimos el apoyo de ustedes a esta propuesta vivimos tiempos en los que se banalizan principios que pensábamos ya consolidados

la igualdad de las mujeres la dignidad de las víctimas de la dictadura y de las víctimas del terrorismo las instituciones democráticas y además de todo ello se banaliza también

y se propone su desaparición la ciudadanía vasca ha entendido esos riesgos y se ha querido blindar así interpretamos que ha querido pronunciarse

en este año así lo ha hecho por última vez el último diez de noviembre

a quienes tenemos distintas formas de entender euskadi y su futuro pero compartimos unos valores que son los que han hecho que lleguemos hasta aquí hasta el momento presente

está habiendo un esfuerzo por poner en marcha un gobierno para el conjunto de españa que preserve

esos principios democráticos y también cómo se recoge en el preacuerdo ya conocido para que las soluciones al problema territorial se hagan con arreglo a lo previsto en la constitución el grupo socialista cree que merece la pena contribuir desde este parlamento a ese esfuerzo de estabilidad y de progreso y la mejor forma de hacerlo es nuestro criterio es destacando que aquí

los intentos por derribar el espacio de convivencia que abre el estatuto

que no se quebrara nunca esta vía que hemos conseguido que desde las instituciones no se echara por la borda todo lo que tanto costó coser para superar la dictadura otros

que no hemos seguido la deriva de cataluña y al saber que en el gobierno de españa va a seguir habiendo una propuesta de diálogo y de encuentro dentro de la legalidad en este contexto es en el que se produce este debate en un contexto de turbulencias pero también en un contexto

y es especialmente oportuno trasladar a esos ciudadanos muchas veces desorientados que sus instituciones contribuyen a la serenidad a la apuesta por el progreso conjunto

y ha costado mucho no hace falta que se lo explique a ustedes mucho llegar hasta aquí jamás los vascos pudieron votar antes de mil novecientos setenta y nueve un acuerdo con este alcance

jamás ninguna votación ciudadana en euskadi ha tenido un apoyo más claro que aquel son muchas razones para celebrar que hayamos llegado hasta aquí

y puede que el futuro no lo sea si no somos capaces de destacar el valor de lo conseguido como mejor base para seguir construyendo sabemos que hay enmiendas de otros grupos sabemos que esas enmiendas recogen posiciones parciales el grupo socialista pide el apoyo

compromiso con el autogobierno compromiso con su desarrollo y compromiso con su actualización de forma viable segura y legal una

amplia que entendemos que debiera poder ser compartida por todos y con ese afán pedimos el respaldo de este parlamento muchas gracias

también nos invita a hacer dos reflexiones por una parte

y nos llena de incertidumbre el hecho de que después de tanto tiempo este estatuto siga sin cumplirse y con muchas competencias pendientes de traspaso

nos interpela hacia la necesidad de renovar esta ley de renovar este pacto de convivencia con el fin de blindar y garantizar derechos y mejorar el bienestar de la ciudadanía vasca hoy cuarenta años después la ciudadanía vasca no se explica por qué sigue

que representa y cito literalmente resoluciones de este mismo parlamento la expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del país vasco y constituye

institucional básica de la que nos hemos dotado o una ley que representa

como punto básico de encuentro de los diferentes proyectos políticos existentes en la sociedad vasca marco válido para la resolución progresiva de sus conflictos y su contribución

o que representa el compromiso que nos debe unir a todos los que reivindicamos la legitimidad democrática de nuestras instituciones todo esto son resoluciones que obviamente hacemos nuestras también y también las generaciones que crecimos bajo el estatuto en muchos casos

que tiene agujeros visibles y en ocasiones diría que incluso imperdonables como la ausencia de mención alguna

ese es el sentido de la enmienda que nosotros hemos presentado hoy enmienda señor pastor igual igual la misma que hemos presentado en el resto

no somos nosotros los que hemos cambiado ni de postura ni de aliados

y lo que hemos conseguido gracias a él un punto que exige al gobierno central que ratifique

un punto que exige que este cumplimiento se conciba como un derecho y un cuarto punto que reconoce la necesidad de renovar

y que nos insta a todos y que insta a esta cámara a seguir trabajando en esa renovación

etorkizuneko beharrak euskal gizarterako y desde elkarrekin podemos hemos demostrado con hechos y con compromisos claros nuestra apuesta por hacer del nuevo estatuto una herramienta social al servicio de la ciudadanía vasca llegando a un acuerdo amplio que haga de este nuevo estatuto un estatuto feminista adaptado a los tiempos que corren

que contemple retos del presente y del futuro como el cambio climático la digitalización la convivencia en una sociedad cada vez más plural y cómo no

y cómo articular el derecho a decidir en definitiva pasar de un texto escrito

todos los colores y matices presentes en nuestra sociedad hoy en día por eso nos preocupa y nos preocupa mucho que tras tantos años trabajando para la renovación del estatuto atrapados en debates tan viejos llevamos años en la misma pantalla y como no consigamos avanzar

sobre la mesa de personas expertas sobre el futuro texto nos hace pensar que algunos partidos parecen más cómodos atrincherados en su discurso de siempre

sinceramente que la sociedad que nos trajo a las instituciones nos exige que trabajemos para sacar adelante acuerdos que nos permitan avanzar y también sobre el estatuto

o nos quedamos con lo viejo lo nuevo o lo viejo en ese sentido queremos reiterar nuestra confianza en el grupo de personas expertas

y nos ha aparecido sumamente irresponsable que su trabajo se haya visto entorpecido por suspicacias por textos paralelos y por filtraciones interesadas

el único fin de fosilizar el debate en las viejas posiciones y evitar que se abran nuevos horizontes de entendimiento eso también aleja

y por eso con actitud constructiva nos abstendremos ante la propuesta original del partido socialista

por pnv y eh bildu pero creemos que es urgente

necesitamos ya un nuevo acuerdo necesitamos ya un nuevo estatuto así que por favor aflojar la sokatira

sí señora presidenta muchas gracias arratsalde on guztioi señor lehendakari

bien hoy señor pastor su iniciativa convendrá conmigo que ha sido superada por la expectativa que ha generado la enmienda que han firmado al alimón

el partido nacionalista vasco con eh bildu porque es cierto que el estatuto de autonomía nuestro estatuto de autonomía la norma más importante de la que a lo largo de la historia nos hemos dotado los vascos

como nunca en nuestra historia no recuperadas sino

de progreso y de bienestar social inéditas en la historia de euskadi

configura esta comunidad autónoma como un sujeto político como una comunidad política

no había sucedido nunca merece ser efectivamente merecedora

construye una cosa completamente diferente que destruye ese reconocimiento no es cierto que nosotros no queramos

y a donde nos están llevando es a un sitio extraordinariamente peor

altera lo que es euskadi porque vacía de contenido la esencia también de lo que es vasco que es apuntarnos una parte de lo que es ser vasco que es ser español amputa una parte de nuestra historia

porque no se entiende la historia de euskadi sin su compromiso con el resto de españa como no se entiende la historia de españa sin

lo que pretenden hacer el partido nacionalista vasco y bildu es que seamos menos vascos es que desfiguremos nuestra condición de vascos

infinitamente peor y ahí efectivamente el partido popular no está dispuesto

lo hacen a través de una enmienda que mencionaba que dice cosas notables y conviene también recordarlo esta enmienda viene a decir aparte de que pide la derogación

de autobuses de bilbao pues va a haber cámaras con reconocimiento facial ustedes firman precisamente el partido nacionalista vasco firma la derogación de la llamada de la mal llamada ley

se conforman ahora con el acercamiento de presos pero dice cosas muy notables también como que

donde nos quieren embarcar es fundamental cito literalmente

competencias necesarias para garantizar los derechos políticos económicos

el euskera en euskadi está apartado marginado no se puede estudiar en euskera este estatuto de autonomía ha borrado la posibilidad de estudiar en euskera porque este estatuto de autonomía o porque no tenemos uno nuevo la cultura vasca tampoco se está pudiendo expandir y nuestra potencialidad económica como no tenemos concierto económico ni cupo pues también está ampliamente perjudicada y necesitamos ir a otro lugar a otro sitio

esto debe ser la post verdad pero luego hay otro punto también muy notable

y partidos políticos del estado y esto lo firman ustedes con estos señores ustedes firman con estos señores a los que son incapaces de sacarles un compromiso en esta ponencia que crearon que ya dijimos que no iba a servir para nada se acuerda usted señor egibar

un solo compromiso por la paz y la convivencia o dicho de otra manera han sido incapaces de sacarles

a estos señores políticos en euskadi y vienen aquí a firmar con ellos que no se quién en el resto del estado que dice no sé qué cosas a esto vamos de verdad esta es la confluencia

y acaban diciendo algo también que no es menos notable y es que además

de alguna manera hay que buscar referencias ya lo intentaron hacer también los nacionalistas catalanes

lo que aquí se propone y dice que además igual que en otros países del entorno europeo

señor egibar o señores de eh bildu díganme un solo país europeo que en sus normas constitucionales

ya lo del eufemismo parecen ustedes la derechita cobarde hablen ya abiertamente de lo que son porque pasamos de pedir la independencia luego la autodeterminación y ahora este eufemismo

no es a ningún derecho que pretenda decidir nos quieren llevar a desfigurar lo que es euskadi y a una independencia de facto que es la que se provoca vaciando

en esta comunidad autónoma que es lo que ustedes pretenden hacer a la luz

llamados expertos y lo que ustedes pretenden

dos dimensiones una que es jurídica y es que lo que pretenden hacer es un objetivo

constitucional hay acreditada jurisprudencia del tribunal constitucional en relación

es un desbordamiento legal se mire por donde se mire

de los preceptos constitucionales en relación con el ámbito competencial es de todo punto de vista un disparate jurídico pero hay una segunda dimensión que no es menor que la jurídica porque la jurídica se dilucidará donde se tiene que dilucidar y ahí esa chapa que usted lleva en la solapa lo recuerda

aquellas cuestiones que afectan al ordenamiento constitucional porque nadie está por encima de la ley tampoco un independentista pero la dimensión política es extraordinariamente importante también y ahí también vamos a dar la batalla porque si alguien cree que el partido popular solo va a dar la batalla en el aspecto jurídico se equivoca

porque aunque a algunos le sorprenda quienes no somos nacionalistas también tenemos sentimientos de pertenencia

y queremos convivir en una tierra convivir con diferentes en una tierra en la que también se reconozca la singularidad

nacionalistas porque además porque además no está escrito en ningún sitio

ni está escrito en ningún sitio ni debe ser aceptado por nadie tampoco debería ser aceptado por los nacionalistas porque

nosotros defendemos que nuestra historia no nos debe de condicionar sin duda pero nuestra historia tampoco se debe de alterar tampoco se debe de manosear

y afirmar que lo que ustedes pretenden hacer recoge ese heredero de una euskadi pretérita

pero es materialmente imposible porque no se sostiene en ningún lugar y algún historiador hay

por eso hay otra forma de entender euskadi que no es la nacionalista

porque no nos limita porque no secciona partes de nuestra identidad porque no nos obliga a elegir si quieres más a uno o quieres más otro porque no tensiona la convivencia entre vascos

y como quieran y como gusten y que se dota de normas en las que no inclina la balanza hacia un lado en detrimento de la otra que es lo que supuso el estatuto de autonomía vigente

mejor no ir si vamos a otros sitio es para mejorar para ensanchar la convivencia para ensanchar los espacios de encuentro para fortalecerlos más

tenemos que quedarnos con la ruptura de los afectos con la ruptura de nuestra historia con convertirnos en menos plurales en menos vascos por desfigurar lo que euskadi es esa complejidad histórica

y nosotros queremos preservar la complejidad de euskadi queremos preservar esa pluralidad extraordinaria que es uno de nuestras principales señas de identidad que forja nuestro carácter

estos con los que ahora usted firma que hay ataques contra los derechos fundamentales ya pretendieron acabar con nuestra pluralidad defendiendo la violencia como una herramienta

para imponer una idea política con los que ustedes hoy van a firmar esto no hace falta irse al congreso de los diputados ni a ningún otro sitio están aquí no podemos falsear la historia tampoco en esto

una patria no vale tampoco ni una bandera vale desfigurar la historia no no lo vale y yo les voy a decir una cosa para terminar porque ya termino gracias señora presidente por su generosidad mire

no creemos que ustedes vayan a conseguir separarnos de españa no lo creemos lo que sí creemos es que nos pueden convertir en cataluña y le puedo asegurar que mientras el partido popular tenga algún tipo de representación y de fuerza en esta cámara y en la política vasca eso lo van a tener ustedes muy complicado muchas gracias

lehendakari andrea mila esker arratsalde on guztioi señor pastor tarde mal y nunca porque

impusieron como festivo a no ser que esta proposición no de ley encierre otro propósito

ni materialmente ni políticamente nada constructivo quiero decir materialmente ustedes han tenido muchos años para completar este estatuto para cumplirlo algunos con mayoría absolutísima pero lo de cumplir la ley ustedes se lo pasan por alto una vez y al mismo tiempo exigen a los demás que la cumplan

que han evitado una y otra vez el cumplimiento de este estatuto ustedes que lo han cercenado a base de leyes básicas del estado utilizando los tribunales en fin utilizando mil maneras en todo caso en euskal herria bildu creemos que lo que está pasando es lo que ustedes quieren que pase porque responde a una relación de subordinación

han incumplido este estatuto y es lo que ustedes quieren celebrar mal por tanto aunque hay que reconocerles el mérito

instituciones y nunca porque nunca proponen nada constructivo se lo he dicho en varias ocasiones en este parlamento

socio sino del fundador del partido socialista obrero español decía el fundador de su partido este partido y lo decía en cortes españolas por cierto

mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita fuera de la legalidad

podríamos acordarnos también de uno de los antecesores de la señora mendia de cuando txiki benegas se manifestaba sujetando una pancarta pidiendo la autodeterminación yo les quiero hoy llamar a la reflexión porque desde puntos de vista

la mejor solución para todos y para todas la que supone una ventaja para todos y para todas es la de un acuerdo que reconozca la existencia de realidades nacionales diferentes a la castellana

su propio futuro como otras naciones lo hacen en europa esta es no solo la mejor fórmula sino la única y definitiva incluso

la única que asegura su futuro cerrando definitivamente un gran problema que arrastra desde hace siglos y que le genera una gran pérdida de energía para afrontar su propio futuro con éxito pasar la página de la represión pasar la página del imperialismo

y ojalá democrático mientras llegan nos opondremos a su iniciativa y estaremos encantados además de que se sumen a la nuestra porque no hay ninguna línea en ella a la que el partido socialista obrero español deba oponerse y lo mismo digo de podemos no hay motivo racional para ello salvo que se trate de una defensa numantina de la unidad de españa pero eso

volver a hincar el diente a partir de la semana que viene reconduciendo las maniobras entre bambalinas de quienes hayan podido pretender hurtar el debate a este parlamento reitero apoyaremos la enmienda y no la propuesta socialista porque

llamado euskal herria existe es una nación y tiene por tanto derecho a decidir su futuro sin tutelas ni vasallajes y tiene derecho a decidir su futuro

también podemos por desgracia ha hecho más hincapié en lo que nos falta que en reivindicación de lo que tenemos y a mí me parece que eso es un error que el gran logro del estatuto

y los socialistas vascos no lo hemos negado nunca pero me parece importantísimo que se reivindique lo mucho que hemos avanzado en este país gracias precisamente el estatuto un estatuto que estos señores por cierto combatieron durante mucho tiempo que necesita mejora y actualización por supuesto

fue apostar por una reforma de la constitución en clave federal y no tuvo ningún éxito porque decían que eso en el clima político que se respiraba en españa era imposible y esto es más fácil estos que plantean ustedes es más sencillo de conseguir políticamente que una reforma de la constitución en clave federal especialmente ahora

que puede abordar la crisis territorial de otra manera me gustaría que pensaran un poquito en todo esto

bildu ha hecho una especie de salto en el vacío

que les cuesta mucho hablar de cuando se aprobó el estatuto por qué se aprobó cómo se aprobó y los

especie de no reivindicar lo hecho bueno yo lo entiendo porque ustedes lo combatieron y lo combatieron incluso con muertos en la calle no y ahora me parece muy bien que se apueste por un nuevo estatus pero por qué no optan ustedes

en clave federal que consiga gestionar la realidad de euskadi

de nación en el estatuto otra cosa es la dimensión que cada uno le quiera dar pero no nos pueden pedir que nosotros comulguemos

y esos conceptos no caben dentro de la constitución y ustedes lo saben perfectamente también los señores de podemos que por cierto tengo que decirles que lo que han firmado ustedes aquí es una cosa y lo que firmaron con el pnv en el ayuntamiento de bilbao es otra distinta

no en función de la institución donde están y del socio con el que pacten y luego a mí esto me ha sonado señora iriarte y señor egibar en una especie de teatrillo es decir yo no sé si creerme cuando ustedes dicen que

porque les ha traicionado y eso son los de verdad unos y otros o son ahora

una propuesta que hasta hace cuatro días rechazaban y escenificaban públicamente en los medios que estaban absolutamente alejados

y de traicionar los compromisos de la ponencia de bases no sé con qué me tengo que quedar con el señor egibar que pacta con ustedes en la ponencia de autogobierno unas bases

con cuál de ambos con qué bildu y con qué pnv me tengo que quedar con lo que dice ahora el señor egibar con las proclamas que el señor urkullu hace y que yo comparto básicamente porque me crea dudas me crea dudas

un escenario de escenificación política para tratar de llevar cada uno el agua a su molino y obtener réditos electorales sinceramente no me parece serio que con este tema se juegue a ese escenario de política de cortos vuelos

creo que tiene señora iriarte pocos argumentos y poca legitimidad para

ni nombrarle porque les tuvo que sufrir a ustedes por desgracia

y el señor benegas es cierto que llevó la bandera de la autodeterminación hasta el mismo momento en que se llegó al acuerdo de la constitución y el estatuto y ahí consideró cumplido un objetivo político y sabe usted lo que decía también un ilustre socialista ramón rubial primer lehendakari de este país del consejo general vasco el estatuto debe ser el lugar donde se defiende principalmente eso es lo que nosotros seguimos defendiendo hasta el momento y yo señor egibar respecto a lo que usted hace la mención que hace

de que usted reivindique en este momento al tribunal constitucional no será tan malo y tan perverso el estado español cuando es capaz de decir que efectivamente como hemos dicho también los socialistas vascos

el derecho a la transferencia del régimen económico de la seguridad social en fin no será este estado perverso que solo busca la humillación del pueblo vasco

que como usted ha podido comprobar hoy cuando se comprueba que efectivamente es un título competencial se reconoce que existe y por cierto tengo que recordarle que en esas conversaciones del señor erkoreka con la señora batet es la primera vez que se ha pactado un calendario de transferencias que después se frustró por otros motivos

y ajenos a nosotros y yo solo les emplazo a que aprovechen estoy seguro de que lo harán la responsabilidad histórica que se abre en españa en este momento para cuajar un gobierno

el debate la reflexión inicial es la misma y ahí empiezo por el señor pastor

porque llegamos a un acuerdo porque trabajamos para llegar a un acuerdo lo que no entiendo es cómo usted saca pecho de quedarse solo en todas las instituciones con el mismo texto

en una sokatira permanente para sacar réditos electorales también

y por lo que no lo trajeron hace un mes que es cuando fue el aniversario del estatuto

berri bat nahi dugulako y en este sentido también me remito al señor pastor nosotros hemos puesto en valor

pero es que si lo que queremos es mirar al futuro tenemos que pensar y tenemos que mirar y tenemos que dialogar y debatir sobre cuáles son

que arreglar de cara al futuro no es excluyente como no es excluyente hablar sobre una reforma constitucional

en una reforma del estatuto ni siquiera una condiciona a la otra creo que son dos caminos aceptables que no tienen por qué condicionarse uno al otro

señor lehendakari fíjese dónde estamos

señores del partido nacionalista vasco a la cámara en general fíjese en qué momento histórico estamos

y en relación con él la situación propia del país vasco después de cuatro décadas

que ha causado un daño extraordinario en el conjunto de esta sociedad

años de un enfrentamiento insoportable de división de bloques irreconciliables hoy euskadi puede mirar a otras comunidades autónomas a otros lugares con una distancia que hace relativamente pocos años éramos incapaces de imaginar

a la bronca que nos llevará permanentemente a buscar lo que nos divide en lugar de lo que nos une una especie de voluntad

de este que nos lleva a buscar la diferencia y a romper los consensos que nos han permitido avanzar a pesar del terrorismo avanzar esos cuarenta años

que objetivamente en su parte sustancial en lo que da herramientas políticas para poder progresar y para poder hacer que una sociedad evolucione está netamente cumplido

nunca las han querido porque no querían convertirse en los carceleros o si hablamos del régimen económico de la seguridad social que esta última sentencia señor egibar no aporta nada ya hay jurisprudencia del tribunal constitucional que dice en qué términos se tendría que

pero a ustedes no les interesa tal y como ha establecido el tribunal constitucional quieren otra cosa y otra cosa que nosotros no compartimos porque pone en grave riesgo la caja única de la seguridad social y por lo tanto a las pensiones de los vascos y por lo tanto su bienestar

debe de estar la sensatez práctica de lo que realmente importa

garantizada en un contexto por cierto lleno de incertidumbres también sobre el futuro del sistema de pensiones y ustedes lo que pretenden hacer es introducir aún más elementos de inestabilidad o de confusión

al final parte del meollo de la cuestión mire yo le confieso que no tengo demasiado apego por las identidades colectivas no lo tengo

cada uno entiende la identidad de una manera pues eso personal porque la identidad en mi opinión es personal

existen identidades perfectamente compatibles y no minoritarias precisamente en esta tierra que conviven con naturalidad cada uno en mayor o menor grado con su condición de español y vasco y usted lo despacha diciendo no entramos ahí cómo que no entramos ahí este es el meollo de la cuestión porque lo que ustedes van a hacer con eh bildu lo que ya están poniendo negro sobre blanco señor lehendakari y que hoy votamos señor egibar cómo no va a despertar esto expectativa

de autogobierno para que ahora nos desayunemos una vez más a pocas horas de que se presenten las conclusiones ya diciéndonos cuáles son que es el derecho a autodeterminación

claro que genera expectación política porque el contexto obviamente no es el mismo claro que lo han votado en numerosas ocasiones en esta cámara en esta propia legislatura y creo recordar que en este propio periodo de sesiones sobre la independencia o en este caso el derecho de la autodeterminación o en este caso el derecho a decidir

pero a tan pocas horas de que se presenten las conclusiones por parte de los expertos todavía adquiere más relevancia

de orden político y señor pastor

cuando usted habla de la sensibilidad territorial que va a traer el señor sánchez de verdad que a algunos nos preocupa aquí la sensibilidad oiga mire

el estado de derecho el ordenamiento constitucional y si la sensibilidad es

amén jesús a lo que sea eso no es sensibilidad eso es irresponsabilidad del señor sánchez

que no a costa de todo no justifica ser presidente del gobierno

que las cosas vayan razonablemente bien y le aseguro que hay compañeros de viaje

que no garantizan precisamente que el destino de ese viaje sea razonable y cada semana que pasa cada iniciativa que ustedes aprueban aquí en el parlamento vasco con estos señores hay menos margen para dar marcha atrás

ni sé desde cuándo pero luego no hacen nada y ustedes han tenido posibilidades de hacerlo una y otra vez con mayorías absolutísimas como le he dicho antes no hacen nada de eso y luego usted habla de sumar qué es lo que suma qué es lo que divide pues yo también le diría que por ejemplo divide la precariedad laboral o la pobreza o la brecha salarial o la diferencia entre hombres y mujeres y ustedes ni aquí ni allá han hecho grandes cosas y bueno divide también el decretazo que ustedes en fin así en plan decreto lo aprobaron ayer menuda carta de presentación para un gobierno que

de progreso o que quiere ser de progreso aunque estemos en los prolegómenos en fin

me encuentro con muchas cosas que dividen mucho esta sociedad

que la ciudadanía pueda decidir su futuro democráticamente y que pueda decidir sobre todas las opciones políticas y ustedes

eso y señor pastor divide aporrear a la gente en la calle eso también y ustedes saben que tienen que abrirse a un estado democrático saben ustedes que es la solución la auténtica solución ustedes saben que el inmovilismo del sistema político español ha sido y es absolutamente irresponsable máxime cuando existen mayorías muy importantes que demandan que quieren decidir su futuro esto es así egibar jauna

baina se planteaba nuevamente por parte de borja semper el tema de bueno pues de los derechos colectivos y demás

la base de la pluralidad política está en que todos los proyectos políticos democráticos

y deben tener la posibilidad de materializar ese proyecto

siempre que tenga respaldo popular y utilice vías democráticas y evidentemente ese es el principio democrático que es el derecho que le asiste también al pueblo vasco porque no somos solo sociedad vasca somos pueblo vasco el derecho que le asiste a decidir su futuro a ser consultado sobre su futuro

determinación libre y democráticamente expresada sea respetada ese

técnico legislativo jurídico está en los derechos históricos habrá que combinar esa tradición

de lo que han sido derechos históricos con la voluntad democrática del presente eso es lo que ha planteado

paccionada pacto con el principio democrático y

en esta cámara claro ya sé que a ustedes no les gusta herrero de miñón pero es

y decía en esta cámara llegó a decir el derecho constitucional o sirve para resolver los conflictos de poder los conflictos de identidad

el futuro del pueblo vasco tiene que ser el que los vascos quieran no se trata solamente de convivir que también sobre todo

y normalización se trata de coexistir cuando menos de coexistir

un estado plurinacional y esas naciones deben poder convivir sin anularse las unas a las otras coexistir desde el respeto respeto a la nación vasca a la nación española a la nación catalana y a la gallega

el lehendakari consejeros parlamentarios para mí pues en estos momentos es una satisfacción anunciarles

vamos a cerrar este pleno con una votación positiva por unanimidad y muchas veces en este pleno hablamos de igualdad y discutimos desde cada uno de nuestros puntos de vista porque

pero cada uno lo enfocamos desde un punto de vista porque vamos a ver yo lo del heteropatriarcado pues como puede que ser que sí pero también más bien que no

es muy difícil coincidir también hemos estado hablando ah bueno les quería recordar el otro día leí en un artículo

y desde luego nosotros no vamos a renunciar a nuestra ideología pero leí y me pareció muy acertado que la mejor forma de escapar a la realidad

y no hace falta que veas la realidad también en plenos pasados hemos hablado mucho de contratación
y como hemos hablado en general isiltasuna mesedez y como hemos hablado cada uno desde nuestro punto de vista pues ha sido muy difícil llegar a un acuerdo

creo que si miramos aspectos concretos concretos colectivos concretos con circunstancias concretas va a ser mucho más difícil

y así ha sido en este caso vamos a hablar un poco del colectivo miren estamos ante dos colectivos que son mayoritariamente femeninos mayoritariamente femeninos y con unos índices de monoparentalidad altísimos

están en circunstancias de temporalidad que van desde unos cinco años que bueno son cinco años pero es que hay personas en este colectivo

ustedes creen que si tuviéramos un colectivo así de hombres esto se habría mantenido

además empleados por la administración pública

yo creo que aquí cuando hablamos de igualdad vamos a pasar de hablar de lo general donde puede ser que no estemos de acuerdo a hablar de lo concreto que seguro que todos estamos de acuerdo bueno no todos ahí veo alguno que no está pero en fin vaya mayoritariamente es por esto que traemos hoy este debate

en realidad creo que estamos todos muy cansados no voy a leer todo pero solo decir que vamos a solucionar el problema de unas personas que son

mujeres que están en una situación difícil

muy alto que además raramente consiguen una jornada al completo porque son personas como las de ayuda a domicilio que ese suele ser un problema

que tienen cinco horas cuatro horas seis horas hablando de personas que justamente pueden ganar algo más de novecientos unocero euros lo cual les impide conseguir ayudas

y eso es la realidad y ahí todos los que abogamos por la igualdad

entonces vamos a resolver este problema y para mí es un orgullo que todos ustedes estén de acuerdo y pues eso de la teoría a los hechos y eso es lo que vamos a hacer hoy y por eso yo nuestro grupo como proponente

toda la cámara muchas gracias eskerrik asko de bengoechea andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldera pasatuz

señora de bengoechea tengo que decirle que no

de que si no le he entendido mal de que el acuerdo es posible

y vamos a lo concreto yo creo que también cuando abordamos cosas concretas como estas

detrás de ella hay evidentemente una posición ideológica otra cosa es que yo crea que usted en el objetivo que le ha traído esta iniciativa y que yo comparto y mi grupo

una posición que no se corresponde con la posición ideológica que su partido político aplica a las políticas en el mundo laboral y en el mundo del trabajo esa

si usted no hubiera hablado de la cuestión ideológica pero no puedo compartir eso pero es verdad yo comparto

con esta proposición no de ley y me alegro de que haya habido un acuerdo el acuerdo era muy fácil a mí me gustaría decir que

fundamentalmente a las políticas de contratación que tenemos en la administración pública vasca que se fundamentan en una temporalidad y en una interinidad

de esas políticas tenemos situaciones como la de este colectivo efectivamente altamente feminizado y de otros colectivos similares que trabajan para la administración pública por eso yo creo

que hay dos tareas pendientes hoy le hemos puesto al gobierno

que yo me alegro de que usted haya tenido éxito con ella señora de bengoechea créame que me alegro le ponemos una tarea muy concreta sobre un colectivo concreto pero yo creo que hay una tarea pendiente también sobre las políticas de contratación

y sobre cómo queremos que se administre el mundo del trabajo de las personas que trabajan para la administración para toda la administración pública

está ahí la ley de empleo público vasco que está atascada y yo comparto que ahí es donde se deberá debatir esta cuestión

comparto también que este gobierno ha incumplido acuerdos con los sindicatos que vendrían abordar cuestiones como estas pero más allá de esto y porque efectivamente también comparto que

de que hayamos llegado a un acuerdo amplio que creo que le mandatamos al gobierno vasco

y que luego tendremos que esperar esos resultados y los grupos que hemos firmado esto tendremos también que trabajar que colaborar y que presionar al gobierno para que eso sea

esta proposición no de ley nace en el seno de la comisión de educación que tuvimos el veintitrés de octubre

ante una comparecencia de dos representantes del colectivo laboral de limpieza adscrito al departamento y

ese debate que mantuvimos en la comisión al pleno del parlamento es cierto y considero que es algo en lo que todos coincidimos que la problemática es complicada de solventar y de atajar no es un puesto de trabajo al uso es un acceso a la administración pública y ello conlleva determinada reglamentación

distintos de los habituales porque para el acceso a la función pública el gobierno tiene reglas y tiene procedimientos determinados y este colectivo de limpieza por cierto como ya se ha repetido prácticamente feminizado en su totalidad existen también otros colectivos que están en las mismas condiciones y que también padecen esa precariedad por causa

y que forman también parte de la comunidad educativa en muchos casos no son funcionarios del gobierno vasco pero entran dentro del departamento de educación

y hay que tratar de evitar que eso no se convierta en una situación de discriminación con respecto a otras personas del mismo departamento al igual que mencionamos en la comisión lo volvemos a decir hoy aquí es que queda abierta la vía laboral

no fijo son de carácter temporal y eso es exactamente lo que provoca la incertidumbre de saber si van a continuar o no en su puesto de trabajo o incluso con qué condiciones se va a producir

la de regular desde el punto de vista de la legislación laboral de la función pública y nos parece interesante también plantear un sistema de consolidación que entendemos que iría por fases

sino para muchos otros que pueden estar en las mismas condiciones y esta consolidación debiera de tener prioridad y poner el foco en aquellas personas que se encuentran más cerca de la edad de jubilación

y un recorrido laboral que no está a la mano de las personas que están próximas a la edad de jubilación

que no es de fácil solución aunque se han planteado alternativas porque los puestos de trabajo tienen características muy específicas desde la función pública

otra de las alternativas pudiera ser como otra más hacer fijos los contratos actualmente existentes de carácter laboral que no son en este momento de carácter indefinido en definitiva lo principal es ser capaces de garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo avance paso y recorrido enorme que se haría en el propio sistema porque independientemente de qué colectivo sea del que estamos hablando

razonable y justo para este concreto problema laboral y en cualquier caso lo que nos parece necesario regularizar de alguna forma esta situación

porque nos preocupa porque responde a problemas de precariedad y de falta de estabilidad porque es una situación de angustia y de precariedad permanente de no saber hasta cuándo va a durar

se han dado otros casos de colectivos con características singulares

y espero que con el compromiso de todos podamos seguir recorriendo ese mismo camino nada más y muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

puntualizar algunas cosas señor hernández sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros que nosotros no tenemos fantasmas sobre ustedes y ustedes necesitan tener un fantasma sobre nosotros porque eso les da como cierta épica

contra ustedes que diga oh cielos que vienen los comunistas

con ustedes como ustedes sí lo tienen con nosotros luego otra cosa vamos a ver el haber traído esto aquí no es un acto de caridad ni es un acto de ay qué pena me dan

hay un verdadero yo creo en muchos parlamentarios

laborales y funcionarios arreglar el problema de la interinidad de los funcionarios

y va a ser un charco en el que se va a tener que meter el gobierno vasco pero va a ser muy difícil de solucionar

porque son contratados laborales de la administración entonces hay muchas más posibilidades de solucionarlo y señora ubera yo sé que lo que usted ha dicho es razonable y lo que sea

con laborales no podemos hacerlo porque lo de los funcionarios va a ser una cosa

pero vamos a solucionar este problema concreto y usted

me pone la solución de este problema y del de los funcionarios y de otras situaciones a calendas grecas a las calendas griegas

o sea se resolverá pasará el tiempo y se discutirá

y la señora que lleva veintisiete años siendo temporal

entonces resolvamos este problema concreto y dejemos el problema de la función pública y el problema de los funcionarios para que lo toree el gobierno vasco porque créanme

el torear el problema de la interinidad de los funcionarios va a ser un follón grande

es que no estemos dentro de quince años otra vez pensando cómo vamos a solucionar el problema de interinidad

y de esa forma no estaremos en el problemón que estamos ahora que probablemente nosotros pues como hemos hecho siempre en este país

quiero recordar tantos otros pero no sé cómo va a terminar

ahora en el charco de los contratados laborales creemos que es mucho más sencillo

para entrar bueno pues hagámoslo así porque el gobierno vasco no permitiría que ninguna empresa tuviera trabajadores

demos ejemplo arreglémoslo y lo de los funcionarios y la función pública y todo eso pues despacito despacito porque va a necesitar tiempo

para responder a la señora de bengoechea porque no tengo ningún fantasma sobre ustedes ustedes no son mi fantasma ya sé que yo tampoco soy

sale a hacer aquí unas afirmaciones que yo no comparto entenderá que yo

y creo que coincidamos en el objetivo de lo que ustedes han traído a esta cámara en mi opinión

dejado a un lado la ideología y nos hayamos centrado en lo concreto para mí son dos cosas que están muy muy vinculadas

yo desde luego no sé a quién se refería usted desde luego yo no considero que la iniciativa que ustedes traen aquí lo hagan por una cuestión de caridad o nada parecido desde luego yo no he dicho nada

que compartimos los objetivos que ustedes traían con esta iniciativa lo que yo he dicho porque usted ha hablado de ideologías es que a mí a mi parecer cuando ustedes

concreta la que hoy han traído a la cámara para nosotros eso se distancia de lo que ustedes han defendido históricamente en políticas laborales en el conjunto del estado y también aquí en euskadi y esa es nuestra opinión

no es ningún fantasma porque algunas de las reformas que ustedes han impulsado en materia laboral

con ampliar la capacidad que hay en este caso en las empresas privadas en la temporalidad aunque hoy aquí estemos hablando de la administración pública por eso yo le digo que en mi opinión no se corresponde con las políticas que ha defendido históricamente y yo creo que detrás de toda posición política hay ideología y estoy absolutamente convencido de eso pero yo me alegro que hoy coincidamos en algo objetivo y hayamos coincidido además

en la redacción concreta pero creo que ahora la parte fundamental y en eso sí coincido con usted

y en nuestra opinión este problema concreto que ustedes han traído hoy a la cámara es consecuencia como dije antes de unas políticas no solo del actual gobierno de todos los actuales gobiernos y nos debemos dar por aludidos todos eh que mi organización política también forma parte de un gobierno

y nosotros pensamos que el problema de la temporalidad y la temporalidad en la administración pública vasca es un problema muy muy grande que viene determinado porque se ha buscado que la estructura sea así